afrontamos la fase definitiva del proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita este proyecto de ley refleja todo el trabajo desarrollado durante el último año y medio tanto desde el gobierno vasco como desde esta misma cámara hoy es un día importante

en este país este proyecto de ley se enmarca en el plan de paz y convivencia aprobado en noviembre de dos mil trece

destaco dos la primera es el apoyo y reparación a las víctimas del terrorismo una iniciativa que da continuidad a la política del gobierno durante cuatro legislaturas

la segunda es el apoyo reconocimiento y reparación a las víctimas

este segundo apartado establece que el gobierno creará las herramientas legales necesarias para desarrollar y ampliar los procesos de reconocimiento y reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos por causa de acciones de contraterrorismo ilícito cuyo amparo no esté dentro de los supuestos que contempla la actual legislación

pero encuentra su antecedente en el año dos mil once más en concreto en la proposición no de ley aprobada por este parlamento el treinta y uno de marzo de dos mil once sobre víctimas de violaciones de derechos humanos

en un contexto de violencia de motivación política esta proposición instaba al gobierno a articular medidas de reparación de estas víctimas así

de declaración y reparación de las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida entre los años mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho esta legislatura

el gobierno anunció un primer borrador para un anteproyecto de ley que diese continuidad

con posterioridad el once de junio este parlamento con los votos favorables de pnv

instó al gobierno vasco a continuar desarrollando las políticas

provocadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial que se vienen impulsando desde la anterior legislatura a raíz de este acuerdo

para la elaboración del anteproyecto de ley este año el veinte de febrero se celebró en donostia un acto de reconocimiento institucional

amparadas por el decreto ciento siete barra dos mil doce que ha permitido reconocer a ciento ochenta y siete personas como víctimas de vulneraciones de derechos humanos causadas por abuso de poder o uso ilegítimo de la violencia policial entre mil novecientos sesenta y mil novecientos setenta y ocho por último

y hoy defendemos este proyecto de ley supone la continuación mediante un instrumento jurídico con rango de ley del camino iniciado

que supuso el reconocimiento y reparación de víctimas desde mil novecientos sesenta hasta mil novecientos setenta y ocho este proyecto de ley en la doctrina de los tratados y acuerdos internacionales declaración universal de derechos humanos pactos de mil novecientos sesenta y seis de naciones unidas

esta base ha permitido avanzar en la definición y protección de una serie de derechos fundamentales de la persona el derecho a la vida y a la integridad física psíquica moral y sexual

indiscutible e intemporal la necesidad de esta ley viene determinada por la existencia constatable de víctimas de graves violaciones de derechos humanos

que no han sido reconocidas ni reparadas hasta el momento es imperativo ético y democrático crear un instrumento para el reconocimiento de estas víctimas que existen tienen derecho a la verdad justicia y reparación

o el matrimonio maría ángeles barandiaran victoriano aguiriano son nombres de víctimas que recordamos entre los años mil novecientos setenta y ocho

la pregunta es estas víctimas existen o no existen sí y por tanto existen familias que han padecido un daño irreversible al sufrir la pérdida injusta

estas víctimas están reconocidas su sufrimiento injusto ha sido reparado de algún modo oficial o institucional sabemos bien que estas víctimas no están todavía reconocidas estas víctimas existen y no están reconocidas nuestra obligación es subsanar esta anomalía y este es el objetivo de este proyecto de ley

mejoras que hagan más solvente y garanticen la seguridad jurídica en el desarrollo futuro de una misma voluntad política

de atender la deuda contraída con la dignidad de las víctimas

dado que desde el dos mil ocho el reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo se regula mediante instrumentos jurídicos con rango de ley parece necesario aprobar ahora una herramienta similar el proyecto de ley contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas a través de un proceso administrativo

la resolución sesenta barra ciento cuarenta y siete de naciones unidas dice que la víctima será reconocida y reparada con independencia de si el autor ha sido identificado

el artículo dos del convenio europeo sobre indemnización a las víctimas dice que la reparación se concederá incluso si el autor no puede ser perseguido o castigado

el proceso administrativo es posible sin necesidad de una sentencia judicial lo primero es atender a las víctimas

no es preciso un proceso penal sino un proceso administrativo el gobierno es plenamente competente en este proceso administrativo esta política de reconocimiento y reparación se inscribe en los títulos competenciales del estatuto de gernika artículo diez punto doce asistencia social

desarrollo comunitario y artículo dieciocho sanidad el objetivo del gobierno vasco es garantizar la seguridad jurídica con esta ley el gobierno ni incurre en inconstitucionalidad ni invade competencias del estado ni sustituye a la jurisdicción penal cumplimos con la obligación de reparar una desigualdad procedemos a reparar desde la asistencia social y el desarrollo comunitario las desigualdades que producen las vulneraciones de derechos humanos

esta afirmación se entiende mejor si situamos la realidad de la víctima como referencia de valor superior este principio tiene un profundo valor pedagógico para la memoria y la convivencia allí donde hay una víctima que ha sufrido un daño injusto hay siempre un acto de reconocimiento crítico de lo ocurrido de reparación la presentación de este proyecto de ley cierra el círculo del compromiso público para completar la construcción de la convivencia desde una visión global y de futuro el mensaje es claro todo terrorismo violencia o vulneración de derechos humanos se deslegitima desde el sufrimiento injusto de cada víctima cada víctima representa la injusticia de la totalidad de las víctimas desde el principio de centralidad de la víctima no cabe la teoría del conflicto ni de los bandos enfrentados para justificar o legitimar una u otra acción no cabe la equiparación de unas violencias con otras o la compensación de unas víctimas con otras

el reconocimiento a cada víctima representa una deslegitimación total de todas las vulneraciones de derechos humanos y una deslegitimación autónoma y específica de cada forma de terrorismo o violencia considero

es un factor de convivencia y de futuro es un principio con fuerza normativa en la legislación internacional también en la legislación estatal y autonómica el proyecto ley que presentamos es mejorable y perfectible ahora bien

hemos elaborado este proyecto de ley con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica así como evitar cualquier recurso

y reparar a las víctimas la construcción de la memoria requiere reconocer críticamente la existencia también de estas vulneraciones de derechos humanos requiere

a todas las víctimas esta es la razón que justifica la necesidad de esta ley es una pieza necesaria para la construcción de una memoria crítica del pasado y la normalización de la convivencia futura biktimaren nagusitasun printzipioa azpimarratuz bukatuko dut

instituciones y partidos políticos tenemos el deber de afrontar este proceso con altura de miras y visión global el deber de seguir avanzando paso a paso

la convivencia y los derechos humanos creo sinceramente que hemos avanzado mucho en buena parte también gracias al trabajo de este parlamento durante años

el reconocimiento de las víctimas la recuperación de la convivencia y el convencimiento colectivo de que matar estuvo mal y que no puede volver a suceder

gracias presidenta buenos días a todas y a todos señores consejeros señor lehendakari

las razones para presentar esta enmienda de totalidad a la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidos en un contexto de represión ilícita en el país vasco entre

y mil novecientos noventa y nueve que paso a defender en primer lugar tengo que decir que el proyecto de ley fue presentado con prisas y de manera

y ello por intereses electorales y partidistas del partido en el gobierno el partido nacionalista vasco llama la atención que tanto el gobierno vasco como el partido nacionalista vasco hayan priorizado la aprobación a marchas forzadas de esta ley a otras que pudieran ser mucho más importantes para la sociedad vasca como puede ser

la ley del sector público vasco la ley de empleo la ley de empleo público entre otras muchas que tendrían una mayor repercusión en la vida

nos parece lamentable que el partido nacionalista vasco haya paralizado tramposamente una posible modificación del reglamento de esta cámara para habilitar de manera permanente enero y julio y sin embargo en este caso cuando le ha interesado por simples intereses electorales

reglamento de la cámara para acortar los plazos de una ley que electoralmente le interesa mientras paraliza ha paralizado leyes ponencias y comisiones

la legislatura la decisión del partido nacionalista vasco y de eh bildu

solicitada por dos grupos políticos solo puede entenderse como lo que es otra cacicada política protagonizada principalmente por el partido nacionalista vasco la decisión de vulnerar los derechos de dos grupos parlamentarios nos parece inaceptable porque además este proyecto de ley ha tardado en llegar años por la desidia del señor jonan fernández y el propio lehendakari ya que la ley podría ser igualmente aprobada

legislatura con calma y el máximo consenso y con todas las garantías jurídicas sin tener que forzar plazos y el propio reglamento de la cámara así se ha entregado finalmente a la cámara en nuestra opinión a medio hacer un proyecto no lo suficientemente trabajado con un buen número de dudas jurídicas no resueltas y conflictos competenciales que si no se resuelven invalidarían finalmente la ley todas las leyes

teniendo en cuenta su polémico contenido más que ninguna otra y no se ha hecho lo suficiente no se ha trabajado lo suficiente para que el proyecto de ley sea

jurídicamente seguro además con este proyecto de ley tal y como estaba inicialmente redactado se avala en nuestra opinión una actuación cuasi judicial del órgano de valoración

en exclusiva al estado el reconocimiento de vulneraciones de derechos humanos al margen de un procedimiento judicial e incluso en contradicción

socava el principio de exclusividad de la función jurisdiccional del estado las resoluciones de la comisión de valoración y también el derecho a la verdad recogido en el artículo

al honor a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado supuestamente relacionados con los casos que se analicen la potestad de la comisión de valoración de requerir tal como se dice a otras administraciones antecedentes datos o informes

los expedientes implica posibles obligaciones a entidades y personal dependiente de la administración general del estado cuando el principio constitucional de cooperación no ampara extralimitaciones competenciales el proyecto deja todo abierto para que esta comisión de valoración pueda dar la calificación de víctima sin todas

dándose de ese modo carta de naturaleza a un procedimiento extrajudicial para decidir sobre cuestiones que pueden ser constitutivas de hechos delictivos cuestiones que la constitución

a los tribunales uno de los pilares del estado de derecho la competencia de investigación y de imponer penas sobre hechos delictivos corresponde únicamente a los jueces incluso se da la potestad a la comisión de valoración para que en el proceso de reconocimiento de víctimas se puedan reestudiar las causas judiciales previas

absolución nos podemos encontrar con que se puede vulnerar el derecho al honor de policías o de otros implicados que en su momento fueron absueltos por la justicia puesto que el órgano al revisar el caso y al considerar al demandante víctima da lugar a que se produzca una condena extrajudicial para el que ocasionó el supuesto daño al que se le ha reconocido

de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia que aquí quedaría totalmente vulnerado al actuarse al actuarse al margen de las garantías que otorga el procedimiento jurisdiccional consagrado en la constitución además el concepto

entendemos que es un concepto erróneo poco claro confuso y muy problemático y así por cierto lo han recogido

en algunas de sus enmiendas tanto de totalidad como parciales la ley da por ciertas víctimas y hechos que no han sido esclarecidos y así lo recoge también algún otro grupo en algunas de sus enmiendas

inexplicablemente además en el texto legal se cita en nuestra opinión innecesariamente a las víctimas del terrorismo de eta cosa que entendemos está fuera de lugar es algo innecesario y provoca confusión no tiene sentido además que se reconozca por vía administrativa como pretende la ley la existencia de vulneraciones de derechos humanos cuando está abierta

judicial el artículo dos punto dos del proyecto de ley señala que a los efectos de esta ley se considera vulneración de derechos humanos producidos en un contexto de represión ilícita

por un lado que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política por otro lado que haya sido llevada a cabo en un contexto de actuación o actuaciones con fines de represión ilícita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

o incontrolada sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad sobre los hechos constitutivos de tales vulneraciones esta última expresión es otra razón más para presentar esta enmienda de totalidad por parte de upyd en fin estas son las consideraciones que yo quería realizar

y en relación también al contenido del mismo y las razones que explican nuestra enmienda de totalidad dicho esto y puesto que estas enmiendas de totalidad van a ser rechazadas

en la ponencia para que todas estas cuestiones todas estas dudas jurídicas todas estas dudas competenciales puedan ser aclaradas nada más y muchas gracias

barrio jauna buenos días

consejeros consejeras no ha sido esta la mejor forma de abordar un proyecto de ley complejo jurídicamente complicado políticamente que necesitaba de espacio parlamentario

dee más posibilidades para los grupos que no son del gobierno sirva también esta enmienda de totalidad como protesta

en lo relativo a la no concesión de ningún plazo de ampliación de enmiendas situación insólita en este parlamento

insólita también en la práctica parlamentaria los retrasos del gobierno lo pagan los grupos parlamentarios las prisas del gobierno

de la cámara protegiendo al gobierno por encima de los parlamentarios ha habido proyectos de ley proposiciones de ley

plan vasco de estadística dos ampliaciones casi un año de tramitación

dos ampliaciones año y medio año y un mes de tramitación mujeres agricultoras dos ampliaciones un año de tramitación

ampliaciones un año siete meses de tramitación espectáculos públicos tres ampliaciones un año y siete meses de tramitación adicciones

un año cinco meses gestión de emergencias dos ampliaciones un año y siete meses tercer sector social tres ampliaciones un año dos meses

fundaciones tres ampliaciones once meses proposiciones de ley

dos años y nueve meses vivienda cuatro ampliaciones dos años y un mes estatuto cargo público cuatro ampliaciones un año cinco meses

cuatro ampliaciones luego aprobaremos la ley dos años y los meses de tramitación

el proyecto de ley que estamos debatiendo cero ampliaciones

meses previsiblemente el día veintiocho se aprobará tres meses de tramitación pues esto mire hasta la ley exprés

de la fiesta tuvo dos ampliaciones de plazo y también seis meses de tramitación incluso esa ley exprés que tanto se necesitaba

hay que protestar es vulnerar los derechos de los parlamentarios

ha presentado siete solicitudes de ampliación de enmiendas que se han concedido a proposiciones de ley en algún caso dos veces a la misma e incluso alguna proposición de ley

como la de la reforma del tribunal vasco de cuentas públicas eso es intolerable a los efectos parlamentarios es sencillamente

desde aquí y no queremos diluir la importancia del contenido de esta ley porque señores del pnv ustedes ha vulnerado los derechos de los parlamentarios en esta cámara

con el estudio bien se podía haber continuó la siguiente legislatura es decir no es una cuestión de tiempo es una cuestión de calidad parlamentaria y aquí ha fallado

bien en otro orden de cosas en el mismo pero ya entrando en las cuestiones que afectan al proyecto ley cuestiones de forma y de fondo hacen que el grupo parlamentario popular presente enmienda de totalidad al proyecto ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de

entre los años mil novecientos setenta y ocho y mil novecientos noventa y nueve y pida la devolución del mismo al gobierno vasco el gobierno vasco

que arranca como se recordaba de compromisos parlamentarios que apelaban como elemento fundamental a la búsqueda de para la reparación y el reconocimiento de víctimas causadas por vulneraciones de derechos humanos cuestiones en las que todos queremos trabajar y todos estamos dispuestos a trabajar el ejecutivo no ha conseguido ubicar el debate

un proyecto de ley de estas características con las suficientes garantías jurídicas y con el suficiente tiempo para que los parlamentarios puedan desarrollar un estudio

completo y elaborar un trabajo riguroso y fundamentado en la posibilidad de la búsqueda óptima de instrumentos necesarios para regular la materia en cuestión

y dificultad debido a una serie de aspectos que no pasan desapercibidos y que todos ustedes conocen un proyecto de ley de estas características

usted lo ha tenido un proyecto de ley de estas características necesita tiempo de estudio y tiempo de análisis por parte de los grupos parlamentarios que así lo reclamen y tiempo para su estudio y debate en ponencia

de eficacia en la búsqueda de soluciones jurídicas a partir de la negociación de las enmiendas y única vía de generar acuerdos y consensos eso está claro consultar la aplicación de estas cuestiones a otras leyes es decir lo que tenemos que ver es si estas cuestiones se han aplicado en otras leyes hemos trabajado y hemos alcanzado

el siguiente punto del orden del día de este pleno lo demuestra el elemento fundamental que guía

garantizar la seguridad jurídica y llevar a cabo una confección legislativa que no corra riesgos de vulnerar otras normativas de carácter superior lo que conllevaría

en ese sentido expertos juristas participantes en los trabajos previos a la apertura del periodo de enmiendas han puesto el acento en esas garantías

sobre cuestiones que el proyecto de ley no aclaraba sobre cuestiones que el proyecto de ley desbordaba jurídicamente o sobre aspectos

recurridos o anulados el gobierno vasco no ha hecho bien su trabajo y quiere trasladar la responsabilidad al conjunto del arco parlamentario

el precedente no solo del decreto cuatrocientos veintiséis barra dos mil trece de dieciséis de octubre impugnado por la sentencia del tribunal superior de país vasco sino también la propia ley foral

del parlamento de navarra nos indica que este proyecto también que comparte algunas características no se asienta aún en unas claves de seguridad jurídica cierta y de respeto competencial exigible

y que eso se pueden tratar trayendo un proyecto de ley adecuado o haciendo un trabajo importante parlamentario jurídico que necesita tiempo que necesita

en el trabajo parlamentario lo cual se va a producir es decir la entrada in extremis en el registro del parlamento del proyecto de ley referido lo que

las dudas en materia de legalidad y de la propia viabilidad y se ha certificado la necesidad de tener un tiempo necesario para completar el análisis normativo del texto con más argumentos jurídicos y de legalidad que busquen una garantía de seguridad jurídica a través de la confección y posterior debate de enmiendas

además los marcos definidos como contexto de motivación política y contexto de actuación con fines de represión ilícita que son los que sustentan el ámbito de aplicación y de actuación procedimental del proyecto ley están básicamente

y con una muy deficiente justificación que avale una actuación cuasi judicial del órgano de valoración regulado y del procedimiento diseñado en la norma llama la atención la ausencia

hipotéticamente a lo considerado contexto de violencia política han sufrido vulneraciones de derechos humanos por consecuencia de la acción de los terroristas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

daños físicos psíquicos y morales de relevancia y que no entran en ninguna categoría

abierto la regulación al conjunto de las vulneraciones de derechos humanos que se puedan acreditar estas cuestiones ya justifican que el grupo parlamentario popular

a través de la presente enmienda de totalidad la devolución del proyecto de ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneración de derechos humanos entre los años setenta y ocho y noventa y nueve pero también hay más cuestiones

debiéramos decir que en el debate jurídico hay muchas más cuestiones y vuelvo a decir antes las dudas jurídicas importantes este proyecto de ley parte de unos presupuestos que consideramos discrepan en alguna medida o pueden hacerlo y por eso

del setenta y ocho el proyecto de ley tal y como está redactado por eso mismo habría que trabajarlo y entendemos que habría que trabajarlo

en la medida en que atribuyen funciones propias de la jurisdicción penal en la investigación de hechos que constituyen delitos penados en el código penal

vulneraciones de los derechos fundamentales como los incluidos en los artículos dieciocho y veinticuatro de la constitución española por otra parte al esclarecer una regulación que tiene una clara naturaleza procesal y jurisdiccional invade los títulos competenciales exclusivos

de la constitución española y respecto a la instrucción se puede infringir y

y veintinueve de la constitución es decir en consonancia con los expuesto algunas previsiones del proyecto

podrían estar afectadas y eso lo podríamos estar debatiendo y discutiendo en un trabajo sostenido de ponencia para arreglarlo lo que discrepáramos jurídicamente en consonancia con lo expuesto algunas previsiones del proyecto estarían afectadas de

específicamente serían las siguientes el artículo dos en su apartado dos ya se ha hecho referencia antes y no me voy a extender porque

en el que se desarrolla el denominado derecho a la verdad porque la difusión de las relaciones de hechos que la comisión de valoración haya considerado vulneraciones de derechos humanos puede violar el derecho fundamental al honor el artículo dieciocho de la constitución y la tutela judicial efectiva

los apartados uno dos y cuatro del artículo quince relativa a la instrucción del procedimiento administrativo también posiblemente en cuestión y algunas otras cuestiones que tienen que ver con

además dichas previsiones reguladoras de un procedimiento en el que podrán constatarse infracciones de derechos humanos al margen del cauce de un procedimiento judicial y si las mismas garantías podrían vulnerar

por ello se necesita señor lehendakari

despejar dudas jurídicas para establecer procedimientos adecuados para que los órganos que se constituyen tengan toda la seguridad jurídica posible y necesitamos tiempo para ese trabajo tiempo

el que ustedes no nos han dado también tenemos que decir que por otro lado hemos presentado cuarenta y dos enmiendas parciales y tenemos que decir una cuestión claro que estamos dispuestos a alcanzar acuerdos y a trabajar contra las vulneraciones de los derechos humanos vengan de donde vengan

el debate sostenido la búsqueda de la seguridad parlamentaria es la mejor fórmula para conseguirlo ello junto al rigor jurídico y de momento no estamos en ese escenario nos lo han puesto difícil nos lo han hecho complicado y por eso presentamos la presente

no se ha dado suficiente tiempo como para que los parlamentarios puedan desarrollar un estudio normativo completo y elaborar un trabajo riguroso el grupo que represento ha realizado

intenso que ha cristalizado además en ochenta y tres enmiendas de calado que amplían el foco de la ley y además le ofrecen mejor blindaje en derecho internacional

tal vez de la pereza con la que enfrenta este trabajo tal vez no salga la ley que eh bildu desea lo que no se podrá decir es que no se ha implicado que no se ha aplicado en que haya una ley los argumentos que utiliza el pp son falaces expertos juristas que han comparecido en comisión han llamado la atención sobre cuestiones que el proyecto de ley no aclaraba

o sobre aspectos que corrían un grave riesgo de ser recurridos y anulados esta afirmación para los que estuvimos en las comparecencias podemos decir podemos constatar que es simplemente mentira los expertos además del partido popular han expresado sus opiniones sobre este proyecto decían que estaba bien armado y proponían simples apuntes superficiales o cosméticos apuntes que de desearse se podrían haber incorporado por medio de enmiendas extraer otra conclusión es manipular sus palabras desautorizarles y poner en su boca conclusiones falsas nos habla el pp del precedente el decreto cuatrocientos treinta y seis barra dos mil trece impugnado por sentencia del tribunal superior de justicia del país vasco claro que lo conocemos

porque hemos estudiado la sentencia que parte de ese procedimiento la doscientos sesenta y siete barra dos mil quince y la hemos tenido en cuenta precisamente para no tropezar dos veces en la misma piedra en cuanto a la amenaza

no es sino muestra de la ofensiva del gobierno del pp por vía de su ministro de interior de bloquear

controlado políticamente leyes adoptadas democráticamente por la mayoría de esta ciudadanía en sus instituciones leyes que

y por eso se lanza una actitud de prepotencia de imposición para buscar atajos a la decisión democráticamente adoptada por la mayoría ustedes que nos han repetido hasta la saciedad que no se deben compensar violencias

o su versión más zafia que no se pueden mezclar churras con merinas

contexto de violencia política han sufrido vulneraciones por consecuencia de la acción de los terroristas o

así como las personas amenazadas víctimas de la persecución por parte de eta

considerar la acción de eta un contexto de violencia política tal vez se tiene que reconocer como un avance por parte del partido popular la segunda apreciación es que estas víctimas no tienen cobertura en la ley integral veintinueve barra dos mil once de víctimas del terrorismo según el artículo tres

terrorista así de amplio deja abierto el abanico en cuanto a los amenazados les da cobertura en el artículo cinco referido precisamente a los amenazados acaso no les da cobertura suficiente acaso consideran que no es suficiente amparo

de dicha ley por último hablan ustedes de inconstitucionalidad porque esta ley se atribuye presuntamente funciones propias

la jurisdicción penal ha estado absolutamente ausente para todas estas víctimas para todos estos casos que ahora pretendemos reconocer y reparar y si alguien duda de ello no tiene más que acudir a las ocho resoluciones del tribunal europeo de derechos humanos condenando al reino de españa por no investigar gravísimas

la inactividad de los tribunales ante estos casos ha sido un patrón ha sido sistemática la impunidad que la administración de justicia ha impuesto estos casos ha sido total

no pretende sustituirla y principalmente porque considero que ninguna víctima del estado renuncia ninguna víctima del estado renuncia a sus acciones legales en ningún momento debido al maltrato que dicha administración de justicia les ha otorgado

otra vía además para su reparación y no lo digo yo

es una obligación internacional imperativa que

a los estados los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario garantizan el derecho de las víctimas a imponer recursos y obtener reparaciones y cito

de que dispone la víctima son el acceso a órganos

órganos administrativos y de otra índole así como mecanismos modalidades y procedimientos utilizados conforme a derecho interno estamos diseñando ese camino administrativo estamos diseñando ese camino institucional estamos haciendo

esas modalidades públicas para dotar de reconocimiento y reparación a las víctimas estamos haciendo derecho interno estamos creando

con apego a esa obligación internacional imperativa imperativa de reparar a las víctimas obligación que parece ser se quiere ignorar

según este principio este bloque de principios y directrices se dice además

los estados han de procurar establecer procedimientos para que grupos de víctimas puedan presentar demandas de reparación y obtener reparación

de esos procedimientos es precisamente de los cuales nos estamos dotando por todo ello concluyo que el argumentario de sus enmiendas a la totalidad no un cúmulo de pereza desidia falsedad

precisamente para negar reconocimiento y reparación a las víctimas del estado ez dut bakarrik aintzat hartu nahi testua

eta sententzia horren nondik norakoak ezagutu gabe alferrikakoa zen legea lantzen hastea no es por tanto señorías un problema de falta de tiempo

de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo nada más y nada menos tardó tres meses en tramitarse y aprobarse en este parlamento

en el registro del parlamento el gobierno vasco ha actuado en este caso con diligencia este proyecto de ley para empezar no formaba parte del calendario legislativo y tiene su origen en dos hitos fundamentales

y el acuerdo mayoritario de este parlamento del mes de junio instando a la presentación de un proyecto de ley que dé mayor seguridad jurídica y reconocimiento a estas víctimas

se conoció el veintiocho de abril de dos mil quince hace un año y

sin conocer su contenido no se podía ni se debía empezar a redactar la ley hubiera sido una irresponsabilidad por parte del gobierno vasco de hecho el proyecto de ley incorpora la totalidad de las conclusiones y de las recomendaciones que establece la propia sentencia y el acuerdo del parlamento vasco citado solicitando al gobierno vasco que presente una ley fue adoptado el once de junio de dos mil quince

y estamos debatiendo ya las enmiendas de totalidad no parece razonable por tanto insistir en la falta de diligencia o de interés

recurrente valga la redundancia por otra parte no cabe

y trabajar el contenido de la ley seamos sinceros señorías los grupos parlamentarios tuvimos el primer borrador del anteproyecto en noviembre del dos mil quince

y desde ese momento el gobierno nos ha informado a los grupos parlamentarios periódicamente

al borrador inicial hemos conocido señor barrio de primera mano el contenido y los cambios que se han ido produciendo por lo tanto no es algo que hayamos conocido cuando el proyecto de ley se presenta en el registro cómo por tanto analizar alegar ahora perdón

el análisis no es un problema de calidad parlamentaria señor barrio es un problema de falta de voluntad política o de falta de interés

ciento sesenta y dos enmiendas parciales al proyecto de ley el segundo argumento de la enmienda a la totalidad del pp es que los marcos definidos como contexto de motivación política y contexto de actuación con fines de represión ilícita están inexplicados

la explicación del significado del contexto de represión ilícita se recoge en el artículo dos del proyecto de ley se considerará vulneración de derechos humanos producida en un contexto de

que se haya producido en un contexto de violencia de motivación política y dos que haya sido llevada a cabo en un contexto de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

este segundo caso es el único que se incorpora ex novo en la ley porque el otro venía recogido ya en el decreto

la tramitación de este decreto se asienta en el concepto de violencia de motivación política

en sus propios antecedentes este concepto permite en primer lugar diferenciar esta figura de la del terrorismo para así en segundo término proceder a una mejor identificación

la violencia en un contexto de motivación política en el caso vasco se produce cuando sus autores son agentes del estado que actúan con evidente abuso de poder o extralimitándose en sus funciones así como organizaciones y grupos parapoliciales que han contado con su apoyo

señorías díganme con sinceridad que eso no ha sucedido en euskadi en todos estos años

esta objeción resulta como mínimo paradójica cuando quien la formula es un partido que denuncia una y otra vez

esta ley permite reconocer y reparar víctimas sin mezclar contextos victimológicos y criminológicos diferentes entre otras cosas para evitar equiparaciones entre acciones de naturaleza diferente las personas amenazadas y afectadas por violencia terrorista deben encontrar una respuesta adecuada en la injusticia padecida en el marco normativo específico que se ha creado en materia de víctimas de terrorismo que lleva un largo recorrido en este país

pero la solución no pasa por la incorporación a esta ley de estos casos algo por otra parte que las propias víctimas rechazarían el cuarto y último argumento del partido popular esgrimido en este caso también por upyd y por el ministerio de interior en su informe es el de la inconstitucionalidad de la ley se sostiene que el proyecto recoge funciones propias de jueces y tribunales y competencias exclusivas del estado

es una copia exacta de otro enviado en el mes de marzo y que fue ya contestado por el gobierno vasco

modificaciones en el proyecto de ley que ya fueron

pero es obvio que el ministerio no se los ha leído el proyecto de ley señala con precisión la competencia que ampara la comunidad autónoma del país vasco en su impulso y desarrollo

la garantía del adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos

y la promoción de las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean efectivas y reales

esta política de acompañamiento de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos como apuntaba

en los títulos competenciales que corresponden a la comunidad autónoma vasca por vía de los artículos

diez punto dieciocho sanidad y particularmente diez punto treinta y nueve

así la ley se sitúa claramente en estos tres ámbitos asistencia social sanidad y desarrollo comunitario

por el reconocimiento institucional y moral que se ofrece al declarar la existencia de víctimas de un sufrimiento injusto

tanto las leyes internacionales estatales como autonómicas subrayan que la víctima será reconocida y reparada con independencia de si el autor ha sido identificado aprehendido juzgado o condenado según la resolución sesenta barra ciento cuarenta y siete de naciones unidas

es aquí y en todo el mundo un proceso administrativo y no penal

si lo que dice el ministerio del interior fuese cierto se estarían cuestionando las políticas públicas de verdad

porque ninguna víctima de una violencia grave podría ser reconocida como tal si previamente no se ha producido un proceso judicial que certifique los hechos la autoría y la culpabilidad

todos los expertos juristas que han comparecido en la comisión de derechos humanos al contrario de lo que se ha manifestado en esta

han coincidido en resaltar la seguridad jurídica del proyecto el propio

desmontó todas y cada una de las objeciones jurídicas que aquí ha planteado el señor maneiro por ejemplo estamos por tanto convencidos

a aprobar un proyecto que no hace sino corregir una injusticia la de todas aquellas víctimas que ni han sido reconocidas ni reparadas hasta el momento a no ser que el gobierno español lo que esté negando es el compromiso democrático que tenemos con todas las víctimas de una violencia injusta si queremos construir un futuro de paz y convivencia debemos entre todos hacer una revisión crítica del pasado

y el partido al que represento ya lo está haciendo y nos gustaría encontrarnos con el resto de grupos en este camino miramos al futuro sin olvidar que en el pasado hubo

pues tiene que estar quieto

legealdi osoan zehar ikusi dugu iraganeko akats berak egin direla entre esos errores el fiasco del último intento en fijar una normativa que atendiera a los casos a los que se refiere la ley fue esa ampliación en dos mil trece el decreto original que precipitó al gobierno con mucho voluntarismo pero sin eso que venimos repitiendo que es imprescindible el rigor el consenso y la seguridad jurídica el decreto socialista

no ha sido cuestionado por ninguna instancia política social ni jurídica

que han sido reparadas dentro de lo que se puede reparar un daño sufrido injustamente y eso ha sido posible porque a pesar de regularse por decreto

se optó por ir paso a paso y creando espacios de confianza

que nunca la han objetado y también con el gobierno de españa con el de rajoy

fue la ampliación posterior que prescindió de estos mimbres la que fue tumbada por el tribunal de justicia del país vasco y fue entonces ese mismo

cuando desde el gobierno se nos anunció que llevaban dos meses trabajando una ley

es un desarrollo ampliado de lo que ya había pero todo se retrasó la hemeroteca no engaña y tanto titular de entonces no acaba de explicar por qué se ha tardado tanto en remitir el texto a esta cámara al final de la legislatura prozedura hau bukatzeko

que dimos en junio del pasado año sin que nadie se opusiera de la otra parte del mandato la del consenso y el rigor se han olvidado como tantas veces

en un ambiente de gran crispación política y de una enorme tensión por el terrorismo se tramitó la ley de víctimas del terrorismo en tres meses como lo han recordado antes

se aprobó tres meses después el mismo día que esta cámara respaldaba

una de las leyes la trabajada desde la responsabilidad y el consenso sigue vigente la otra la que se trabajó desde el prurito y la división acabó anulada

final y busquen un consenso amplio no porque cualquiera pueda estar tentado a colgarse una medalla porque las víctimas necesitan certezas y respuestas seguras no escenarios de confrontación y frustraciones por eso hemos votado en contra de la devolución del texto para ofrecer una última oportunidad de lo que ocurra en estas dos semanas dependerá

insisto de lo que ocurra en la ponencia depende nuestro voto final eskerrik asko eskerrik asko

gracias presidenta ya en su momento hace más de dos años apoyamos la toma en consideración de la proposición de ley de

iniciativa presentada por eh bildu texto semejante a la ley andaluza la primera de este tipo aprobada en españa hoy votaremos a favor de la ley nos encontramos ante una ley que finalmente y tras los trabajos en ponencia y en comisión en los que ciertamente upyd

de la acumulación del trabajo parlamentario consagra los derechos de los enfermos terminales garantiza el máximo respeto a la autonomía del paciente en el proceso de delimita las obligaciones del personal sanitario y refuerza el papel de la unidades de cuidados paliativos para cuidar a los pacientes

clínica sanitaria y asistencial si rechazan de forma voluntaria y deliberada la información deberá respetarse esa decisión el paciente terminal podrá rechazar una intervención o interrumpir un tratamiento e incluso en contra del criterio

pueda poner en riesgo su vida podrá elegir recibir los cuidados paliativos en el hospital o en casa y en el caso de que elija morir en un centro sanitario la ley garantizará que pueda estar en una habitación individual hasta la fecha ya existían cauces para hacer posible la dignidad del paciente en el proceso de muerte como son

esta ley perfecciona y facilita todo el proceso gracias a la ley se instaura el derecho a recibir cuidados paliativos incluida la sedación

en que sea ingresada la persona además se procurará facilitar los medios necesarios para que los familiares o cuidadores puedan recibir ayuda específica y se evitará que la atención en cuidados paliativos sea diferente según el centro se trata de que en el proceso final de la vida no haya encarnizamientos innecesarios tratamientos prolongados

hoy contamos con los medios necesarios para ello con la preparación de los profesionales y con la conciencia social que nos empuja a dar adelante por tanto la ley supone un avance respecto a la normativa de la que disponemos y contará con nuestro voto sin embargo el texto

asistido el grupo socialista se ha reservado tres enmiendas

a estas importantes cuestiones upyd va a votar a favor de esas enmiendas del grupo socialista en el segundo congreso ordinario de upyd aprobamos una resolución que literalmente decía lo siguiente proponemos avanzar en la regulación legal del derecho a la muerte digna es decir a disponer el final de la propia vida sin sufrimiento adicional o eutanasia

no puede decidir y actuar por sí misma a consecuencia de cualquier impedimento físico necesitando del auxilio de profesionales de la salud para dar fin a un sufrimiento insoportable la regulación de este derecho deberá tener en cuenta la máxima protección jurídica del solicitante y del profesional dispuesto a auxiliarle

y reiterada con plena información y coincidencia del afectado y del personal sanitario upyd apoya la ayuda a morir sin sufrimiento en aquellos casos en los que el interesado no puede provocar su propia muerte es decir vamos

ha concluido y coincidimos con la definición del concepto de eutanasia que propone la asociación por el derecho a morir dignamente y en general con lo que han reconocido la mayoría de las legislaciones de países donde se ha avanzado en esta canadá bélgica varios estados de estados unidos donde se asume el suicidio asistido por un profesional que receta los fármacos necesarios para poner fin a la vida por el propio interesado o con el auxilio de terceras personas

canadiense que legalizó el suicidio asistido que me sigue pareciendo paradigmática y que merece ser recordada también en el debate de hoy el derecho a la vida no debe transformarse

de vivir esta ley que vamos a aprobar supone un avance pero no un gran avance porque en gran parte lo que se recoge ya se está haciendo

la seguridad jurídica de los profesionales y que los pacientes tendrán un derecho claro a pedir que no se les administren determinados tratamientos para prolongar la vida

de ley a lo que básicamente se está haciendo dormir antes de morir para no sufrir que es otra de las frases típicas de los grupos y personas defensoras de la sedación

hoy euskadi se va a incorporar a la lista de comunidades autónomas que ya han elaborado leyes de estas características primero fue andalucía y luego aragón

nosotros en todo caso abogamos por una ley nacional que fuera más allá de lo que llega esta y por la modificación del código penal para despenalizar

asistido y retiramos todas nuestras enmiendas porque básicamente su sentido está recogido en el texto aprobado por la ponencia y la comisión

algunos extremos de las unidades y profesionales de los cuidados paliativos pero seguramente en el día de hoy estas cuestiones pueden ser consideradas ya cuestiones menores como digo apoyaré las enmiendas socialistas que tratan de automatizar la aplicación de la eutanasia y el suicidio asistido en el mismo momento en que se reforme

realmente esto es lo verdaderamente importante reformar el artículo ciento cuarenta y tres del código penal que castiga con penas de hasta seis años de prisión

enferma esta es la cuestión esto es lo que queda pendiente esta es la reforma que los grupos políticos con representación en el congreso de los diputados deberán llevar a cabo cuanto antes lo dicho apoyamos la ley por las razones expuestas porque da seguridad jurídica a los profesionales y garantiza el derecho de todos los ciudadanos a tener un proceso final de la vida digna y sin sufrimiento upyd ya digo aboga por ir más allá y avanzar hacia una legislación en la que se despenalice la eutanasia y el suicidio asistido en toda españa con la máxima seguridad jurídica

pueda decidir sobre su vida y sobre el momento y la forma de poner fin a esa vida

buenos días de nuevo a todos y a todas bueno es una evidencia que la muerte constituye la única certeza

se viene produciendo una participación cada vez mayor del sistema sanitario en el proceso de morir aunque no siempre de la manera más adecuada pero se avanza mucho y se ha avanzado mucho reconocer la naturalidad de la muerte y procurar la paz al final de la vida deben entenderse como elementos de nuestro patrimonio

también de la organización sanitaria en este caso pero bueno de toda la sociedad es necesario dotar

los profesionales sanitarios del apoyo la información y de las herramientas necesarias para asumir su papel con seguridad reducir la complicidad en una situación dolorosa y compleja como es el final de la vida

ineludible con ellos y un compromiso decidido con la ciudadanía el desarrollo científico o técnico que la medicina experimentó en el último siglo ha supuesto un progresivo aumento de la esperanza de vida un envejecimiento de la población

enfermedades crónicas degenerativas oncológicas este gran desarrollo tecnológico ha supuesto una mejora de las condiciones de vida de las personas y la capacidad de prolongar

este enfoque de la medicina es uno de los responsables de que muchas y muchos profesionales sanitarios se encuentren a veces incómodos e inseguros

por otro lado la progresiva toma de conciencia de la propia autonomía de las personas y el deseo de tomar decisiones relativas

ha calado en la conciencia colectiva es decir se ha avanzado mucho se ha avanzado también bien y desde luego

clara no y debemos de hacerlo también en el ámbito

bien nosotros votaremos a favor del texto votaremos a favor de la proposición de ley de proceso final de la vida bueno hay una

el texto a otras legislaciones que ya están en marcha en otras comunidades autónomas también en cuestiones

garantizar ese proceso final de la vida en las mejores condiciones y de alguna manera entendemos que la proposición de ley la ley que vamos a aprobar lo garantiza

no se ha actuado desde luego no hay ámbitos de actuación contra la legislación básica la legislación del estado

en relación con la inclusión en esta proposición de ley en esta ley definitivamente de ámbitos

afortunadamente desde nuestra consideración esas cuestiones no se tratan en esta futura ley en ese sentido para nosotros sí que es

que pone orden en algunas cuestiones

fundamentalmente retiradas en función también de los debates y de la

nosotros también anunciamos que lo importante ha sido

la seguridad jurídica efectivamente la profundización de los derechos del paciente poner una ley

en la práctica profesional en otras normas en el buen hacer de los profesionales en ese reconocimiento y en ese sentido yo creo que podemos entender que hemos avanzado por ahí la proposición de ley ha sufrido variaciones reordenaciones

de las enmiendas ha tenido que ver con artículos con la

con definiciones con procedimientos con lo relativo a la cuestión profesional y desde luego ha quedado un tanto alterada

al principio el espíritu que lleva nuestro grupo

garantista acorde con el resto de como he dicho antes de la legislación

de voluntades anticipadas pues hay cuestiones que afectan de autonomía del paciente

elemento fundamental con los buenos usos con los criterios médicos y científicos fundamentalmente y con el respeto al paciente y allegados nosotros vamos a anunciar la retirada de nuestras enmiendas pero sí que pediríamos si puede ser

aunque en su día supuso un gran avance en la asunción de esos principios por nuestro sistema de salud la práctica ha demostrado que en algunos casos la ley

resulta insuficiente no estamos de acuerdo no nos parece que resulta insuficiente

cuando se aprobó en dos mil dos yo creo que valorarla en una exposición de motivos de una nueva ley como una ley insuficiente yo creo que no es justo en ese sentido si la presidenta lo permite pues ese artículo catorce

aunque en su día supuso un gran avance podemos votarlo separadamente del resto de la ley nosotros se lo agradeceríamos y ahí nos abstendríamos
muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

muy bien muchas gracias presidenta buenos días a todos lehendakari consejeros

a pasito lento no adecuamos el ritmo de nuestros pasos al de la sociedad hoy vamos a aprobar una ley que podría haber servido para ampliar derechos individuales y que quedará simplemente en una notable mejora existencial

tres enmiendas solo tres enmiendas y vamos a apoyar el resto del articulado de la ley porque como ya adelantamos en el debate en comisión entendemos que el texto

trabajado con total implicación y en la certeza absoluta de sacarla adelante mejora sustancialmente la regulación que teníamos hasta ahora mejora la asistencia que vamos a recibir en el momento final de nuestras vidas

y otorga mayor seguridad jurídica a prácticas médicas que se vienen aplicando ya con las personas enfermas terminales pero también lo dijimos

a la garantía de la autonomía de los pacientes y eso se podría haber mejorado de manera importante modificando expresiones que dejan

a que la última voluntad personal pueda ser sustituida por voluntades e interpretaciones ajenas señorías bildu nos traía una proposición original muy bien intencionada y que a nosotros nos pareció desde el principio insuficiente lo debió pensar también bildu porque de hecho se auto enmendó en la misma línea

a la eutanasia el derecho al suicidio asistido y el observatorio

estuvieron presentes y se mantuvieron abiertas hasta la última reunión de la ponencia no sé qué pasó entonces para que cambiara bildu de posición y explicara públicamente que ese reconocimiento podía generar inseguridad jurídica es curioso

de nosotros o incluso de upyd al que le agradezco ya desde ahora su apoyo a nuestras enmiendas es curioso

sumado una mayoría como ya conseguimos en la ley de vivienda para ampliar derechos y que se haya renunciado a ella

en relación con el debate que hubo en comisión y lo voy a hacer ahora no en el último porque si no luego pasa lo que pasa que cada uno

del debate de manera torticera que es lo que ocurrió en comisión la posición que defendemos

para que quede claro lo digo para quien hoy nos pueda repetir en su caso que la despenalización estaba expresamente recogida en nuestro programa electoral de las últimas elecciones desviando como decía esa atención

de esa manera interesada y sobre todo torticera pero le voy a dedicar unos segundos a esta cuestión se suele repetir mucho que determinados partidos tenemos nuestro centro de decisión en madrid y lo que se quiere decir con eso es simplemente que somos menos vascos es lo que se quiere decir tengo que decir que esta posición ha sido decidida con total autonomía por el partido socialista de euskadi

extensiva al resto de formaciones políticas a las que seguimos apelando y también al resto del partido socialista obrero español no sé si cuando algunos hablan de agenda vasca se refieren a estas cosas

a la ciudadanía vasca a mí que soy vasca a ustedes que son vascos y la llevaremos a defender donde sea por eso

presentamos nuestras aportaciones en las que como les decía parecíamos coincidir con bildu por eso también provocamos un debate de intenciones que dio lugar hace un año

un ochenta y cinco por ciento de los representantes de la ciudadanía vasca es decir un ochenta y cinco por ciento de nosotros pudiéramos y pidiéramos la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido

en qué parte del camino nos hemos descabalgado de esa aspiración de ampliar nuestros derechos civiles en qué parte del camino sí a usted le apelo directamente señora ubera los socialistas no queremos apearnos de la extensión de nuestras libertades y por eso mantenemos estas tres enmiendas

la vida de las personas la vida de las personas

y eso lo hacemos garantizando nuestro derecho o intentando garantizar nuestro derecho a morir de la mejor manera posible que no es otra que morir como queramos

finalmente desde el máximo respeto a los derechos las libertades y la autonomía de las personas ofreciendo la oportunidad

dignidad humana y si tenemos garantizado esto no solo seguro que moriremos mejor

seguiremos siendo personas con capacidad de decidir con una voluntad que respetar no tendremos ni tenemos nunca experiencia propia sobre la muerte pero lamentablemente todos los de aquí presentes hemos

y esa experiencia y la certeza de nuestra propia provisionalidad de que estamos aquí de paso

estoy segura quiere más o menos cómo sea

nos morimos solo una vez y es para siempre señorías o sea que hay que hacerlo bien y la única manera de hacerlo bien es con respeto absoluto a nuestra voluntad y con derecho a que se respete nuestra dignidad y nuestras decisiones yo no conozco otra manera de hacerlo por eso es que queremos que se reconozca el derecho de las personas de todas

que puedan decidir cómo cuándo dónde y con quién morir que puedan decidir hasta aquí he llegado no quiero más no quiero más sufrimiento esto se acabó

con un deterioro irreversible quiere morir y lo pide de manera indubitada en el momento o bien si no puede hacerlo en ese momento con una declaración de voluntad anticipada no hay vuelta de hoja señorías hay que ayudarle a morir hay que garantizar ese derecho porque no estamos en disposición obviamente de garantizar ni la solidaridad con los enfermos ni la generosidad ni la piedad somos una sociedad un poco

cuántas veces hemos utilizado señorías esa expresión

los socialistas queremos una muerte en paz una muerte tranquila serena

pero también para los que se quedan queremos en definitiva ampliar derechos y cada ampliación de derechos

ha venido siempre precedida de debates éticos pasó con el derecho a que cada cual elija si quiere casarse

pasó con el derecho de que cada cual elija compartir su vida con quien quiera sin más límite que la voluntad

también pasó con nuestro derecho con el derecho de las mujeres a decidir cuándo ser madres

pensábamos que era posible que el texto que aprobamos hoy el que se publique en el boletín oficial dentro de unos días podía ser algo más que una notable mejora asistencial que consiguiéramos más derechos poniendo también nosotros las cautelas porque no se nos ocurriría poner jamás en la vida el riesgo de proceso penal a quienes colaboran con harto dolor de su corazón con más allá de todos los pesares en la última voluntad

pero parece que hoy no hay una contundente mayoría de este parlamento vasco que no ha querido que fuera así pero antes de que

quiero que miren dentro de ustedes mismos miren en su corazón miren dentro de ustedes por favor y piensen si hay algo más importante

que mejorar la vida de las personas pero de verdad no como una frase hecha esto es como diría el señor maneiro que tiene mucha costumbre uno de los debates más importantes que se están celebrando en este parlamento estamos hablando de la vida de la gente y si la respuesta es sí

sigan el impulso de su conciencia y voten estas enmiendas y si finalmente pasa lo que se prevé

una sensación agridulce de esta sesión todos respaldamos efectivamente una ley que es un avance sobre lo que teníamos

osadas de las leyes valientes la del aborto la del matrimonio igualitario todas esas leyes nacieron bajo la amenaza de recursos

que cualquier otra cosa hoy nos quedamos esperando que sean los jueces los que sigan solucionando los problemas que tenemos con este

interpretaciones de la norma para evitar la cárcel la prisión

acuerdan atender con muchísimo dolor la última voluntad de sus parientes de sus allegados porque un juez tuvo que intervenir

clamaron en público con una ley de muerte digna clamaron en público desesperada que pararan el sufrimiento y rogó que ayudaran a su hija morir hoy podríamos estar hablando de muchas experiencias

sentimos el mismo estremecimiento ante un montón de casos que vemos en fin casos desesperados que nos salpican cualquier día desde la página de cualquier periódico nos estremecemos con esos ciudadanos porque nosotros también somos

somos los ciudadanos que conocen esos testimonios los ciudadanos que realizan esos testimonios este parlamento no ha querido atreverse a dar un paso importante es una pena lo que rodea a la muerte sigue siendo

por la que pasen aquellos que quieran por la que nadie va a verse obligado a pasar

no me refiero a los socialistas me refiero a las personas señorías volverá a ser tarde para muchos pero como escribió benedetti la victoria

por lo tanto esta ley es positiva porque completa

porque para nuestro grupo es fundamental garantizar el respeto de la autonomía de la voluntad

garantizar también su dignidad en todo momento y especialmente

garantizar su derecho a recibir información y a prestar el consentimiento informado el derecho

cuidados paliativos que requiera su situación y le ayuden a aliviar el sufrimiento y le ayuden a paliar el dolor

así como sus valores o creencias su intimidad y el derecho al acompañamiento de los familiares en esos últimos momentos

que realmente sirva para mejorar la atención la calidad de la atención a las personas en el proceso final de la vida

es un paso lento pero firme tenía dudas respecto a la garantía del respeto a la voluntad de los pacientes yo creo que en esta ley

y preguntaba qué ha cambiado respecto a la proposición no de ley que se aprobó prácticamente hace un año en esta cámara yo creo que es muy importante conocer cuál ha sido la visión o las aportaciones que hicieron en su día las personas que comparecieron aquí precisamente una persona como fue pablo simón

la primera ley en esta materia que se aprobó en andalucía

es verdad que para mejorar la vida de las personas

no es los discursos bonitos

pero también se hacen con leyes eficaces y realizables

en el debate de esa pnl reconoció que existe una serie de límites unos límites competenciales

precisamente para intentar abolir esos límites

discurso pero no ha quedado claro el contenido de las enmiendas que mantiene no ha explicado el contenido de las enmiendas que mantiene y que son precisamente las que nos suscitan muchas dudas

hablan de que los cuidados consistentes en ayuda médica para morir se garantizarán una vez que se reforme el código penal despenalizando la eutanasia y el denominado suicidio asistido no nos ha quedado claro el contenido de la enmienda

es una enmienda ad futurum es que creo que es muy importante que quede claro

en cuanto a técnica legislativa cómo es posible defender esa enmienda

con el planteamiento que hacía el señor maneiro que planteaba

para poder conocer de qué estamos realmente hablando beraz gustatuko litzaiguke azaltzea

sí gracias presidenta ya he explicado en mí primer turno las bondades y las que incorpora esta ley que vamos a aprobar y las razones por las cuales votaré a favor del texto acordado es un día importante se ha dicho

mucho más importante tenemos una buena nueva ley sobre el proceso final de la vida pero una ley que podría haber sido mejor

o supone un paso corto pero firme yo creo que es más corto que firme ciertamente y que hemos dejado pasar una oportunidad para haber alcanzado un texto más avanzado y más progresista hemos alcanzado

por utilizar el mismo término utilizado por la señora ubera pero algunos pretendíamos subir hasta la cumbre o al menos unos cuantos metros más

más parlamentarios progresistas para seguir ascendiendo salvo los diez parlamentarios socialistas que efectivamente sí que estaban dispuestos a ir

legal digamos que insuficiente consensuado

bildu y que será aprobado por todos ciertamente pero un texto legal claramente

y no se ha querido digamos que eh bildu y el partido nacionalista vasco se han acomodado mayoría para aprobar el texto y han preferido dejar de lado otras enmiendas en concreto esas enmiendas socialistas que podrían haber mejorado la ley ya digo que el texto legal introduce ciertas mejoras todos lo hemos reconocido pero se ha renunciado a el pacto pnv y eh bildu ha impedido que vayamos a tener una ley más avanzada se ha preferido incomprensiblemente dejar fuera la regulación

asistido más allá de los límites competenciales que perfectamente conocemos creo que lo que todavía sigue pretendiendo incorporar el grupo socialista

aprobación sino que perfectamente podría ser entendible y aprobable por una mayoría de grupos de esta cámara no se ha querido creo que en este caso sí que podemos decir que por simple pereza y comodidad por parte de los dos grupos principales de esta cámara lo ha dicho antes la señora gallastegui

no hace demasiado una iniciativa para pedir la despenalización de la eutanasia y del suicidio asistido a través de la modificación del código penal cuando ha llegado el momento de legislar el partido nacionalista vasco y eh bildu se han echado para atrás y se han conformado con una ley se queda corta creo que la cuestión o la disyuntiva es si la vida nos corresponde nos pertenece a nosotros y podemos disponer de ella o si nos ha sido dada

y por tanto no nos corresponde a nosotros qué hacer con ella creo que esta es la disyuntiva que está detrás de este debate si la vida nos pertenece a nosotros

nosotros creemos que es un derecho no una obligación y puesto que somos supuestamente seres libres debemos ser libres para decidir cómo vivir y cómo morir mejor el derecho a la vida no debe transformarse en obligación de vivir es decir es no una obligación y añado una frase de fernando savater sobre la que si quieren ustedes pueden reflexionar la cuestión no es si hay vida

buena porque va a avanzar en los derechos de los pacientes en el proceso final de la vida de las personas de todos nosotros pero yo creo que sobre todo

lo que pueden regular y hay cuestiones que no pueden regular y las enmiendas del grupo socialista no pueden entrar en una ley sin que causen conflicto jurídico político y por eso mismo lo que hay que aconsejar a los grupos parlamentarios que defienden esa cuestión

cambien lo que se puede regular allá donde se puede hacer y entonces actuaciones parlamentarias en otros sitios en el congreso de los diputados a través de las iniciativas de su grupo parlamentario

de impulso o de iniciativa parlamentaria de este propio parlamento tendría que ser en la siguiente legislatura pero allá donde se pueden cambiar lo que nos hemos concentrado es en hacer

que avance que mejore la situación actual en relación con los profesionales con el sistema con las organizaciones con los pacientes con las personas que les rodean con el proceso final que sea más claro más definido ese es el elemento fundamental

las enmiendas del grupo socialista o haber aprobado algunas de las enmiendas iniciales del grupo

hubiese sido no hacer una buena ley hubiese sido crear un conflicto político un conflicto jurídico y desde luego hubiese sido un elemento de retroceso
si hay que cambiar algo que se cambie donde se pueda cambiar muchas gracias eskerrik asko barrio jauna euskal sozialistak

gracias presidenta buenos días de nuevo es una pena que tenga que perder un poco de mi tiempo en explicarle señor

cuál es el contenido de nuestras enmiendas porque leyendo queda claro pero meridianamente claro pero lo voy a leer por si hay alguien que todavía duda porque yo creo que incluso las redacción es absolutamente

nosotros décimos en nuestra enmienda una de las reservadas todas las personas que se encuentren en el proceso final de su vida tienen derecho a la protección de su dignidad tal tal tal

se garantizará su derecho a decidir libremente sobre las intervenciones y el tratamiento a seguir y se incluyen la sedación paleativa continuada que sí se ha recogido y nosotros la ayuda médica para morir la ayuda médica para morir desde el punto de vista jurídico

en otras legislaciones en derecho comparado recogida así

es y digo después y décimos después los cuidados consistentes en ayuda médica para morir que son

una vez se reforme el código penal despenalizándolos el suicidio asistido y la eutanasia y la disposición transitoria

yo no sé donde ha visto usted un problema pero no veo ningún conflicto jurídico no he visto ningún sitio en que no se pueda establecer una disposición

los cuidados consistentes en ayuda médica para morir se garantizarán una vez que se reforme el código penal despenalizando la eutanasia y el denominado suicidio asistido de conformidad con lo establecido en el artículo de esta ley

que después de que el ochenta y cinco por ciento de este parlamento decida que hay que ordenar al gobierno de españa que se modifique esto va a ocurrir

yo creo que esto ha quedado claro desde el punto de vista jurídico no veo ningún conflicto a la hora desde el puro en fin de darle forma jurídico formal

jurídico positivo de este país qué problema hay es que qué es esto se garantizará una cama no se procurará garantizar

yo creo señora ubera que hay que aprender hay que aprender de los errores

me voy a centrar en lo principal que es que usted habla constantemente de que se garantiza es lo único que ha repetido por activa y por pasiva y

que se garantiza la autonomía del paciente de todos los pacientes si yo

solo quiero que me responda cómo me garantiza mi voluntad de morir cómo me la garantiza usted

casi me ha salido como lola flores como me maravillaría yo no me la garantiza usted de ninguna manera y

se ha bajado de donde tenía que mantenerse porque hubiéramos tenido una ley muy progresista que hubiera garantizado los derechos de todas las personas

y usted no ha hecho lo que tenía que hacer desde el punto de vista parlamentario para buscar los consensos necesarios para que esta ley salga adelante de hecho hoy

nosotros y upyd pero upyd tienen ustedes un problema para hablar con upyd es decir hablar con upyd le produce menos problemas que los problemas de la ciudadanía traducido al esperanto

es que ustedes se han bajado de una ley que garantizaba derechos para las personas

ni de reclamar derechos de no sé qué en no sé dónde porque usted firmó

en llevar una ley nuestra desde el parlamento pero que con las mayorías que teníamos era imposible aquello oiga señora ubera esa es la razón

era plantear un en fin nosotros no tenemos ningún problema de ese tipo ningún problema de ese tipo lo que queremos es garantizar que las personas vivan mejor y en este caso que mueran mejor

cómo garantiza usted el derecho de una persona que quiere morir cómo garantiza usted el derecho de una persona que quiere ayuda para morir

oiga usted no quiero más cómo garantiza usted ese derecho cómo lo garantiza esta ley si me lo explica yo vuelvo aquí y públicamente le digo que me parece estupendo

liderraren hitzak no creo que se pueda ser demócrata y defender el derecho a decidir

promulgar una ley de muerte digna y de cuidados paliativos

si en la próxima legislatura si en la próxima legislatura hay un consenso al respecto abriremos el debate sobre la eutanasia hau da

es posible poner una disposición transitoria para que entre en vigor cuando se modifique el código penal sin necesidad de modificar la ley del parlamento vasco

ve posible etcétera etcétera le preguntó lo mismo y le respondió claramente

va a ser impugnado directamente y le recordó ya habéis instado ese debate ya está la proposición no de ley

lo de introducir disposiciones transitorias no sabemos qué recorrido legal tiene pero

porque no puede otra cosa es si se quería o no se quería y le recordó

tuvimos una voluntad real de legislar para mejorar el marco normativo de la atención

pero es que aparte le añadió queda mucho por hacer en el campo de la atención al final de la vida

suicidio asistido él era partidario de abrir el debate como lo somos todos pero más importante

ese yo creo que ha sido el objetivo de nuestro grupo a la hora de tramitar esta ley de hecho le puso un ejemplo muy gráfico el ejemplo de bélgica en el que le hablaba de que una vez que se ha conseguido garantizar este tipo de atención

también lo hace pero lo primordial lo primero es que tiene que existir tiene que estar garantizado

que garantizamos en esta ley lo otro pues se lo decía antes

lo ha leído usted pero los cuidados consistentes en ayuda médica para morir se garantizarán una vez que se reforme el código penal qué significa eso

cuando se modifica el código penal ya pero mientras tanto sería lo mismo que esta ley que la ley que se aprueba entonces es a lo que me refería en que no entendemos realmente

el objetivo real de mantener esa postura y sobre todo de traer este discurso a este parlamento cuando no nos compete nosotros lo que no vamos a hacer es actuar de manera contumaz ni perdernos en debates estériles

pero que realmente no llevan a ninguna aplicación práctica de ninguna ley

bozkatu ditzakegu no perdón el párrafo catorce

vale orduan bozkatuko dugu zioen azalpena la parte que queda quitando

buruzkoaren adierazpen parlamentarioa el parlamento vasco hace suya la declaración parlamentaria aprobada en la conferencia parlamentaria global sobre población y desarrollo y la que es previa a la cumbre del ge siete en tokio